en la pasada legislatura desde el diálogo y el consenso hemos sido capaces de impulsar políticas e instrumentos para sacar adelante una política de memoria integral para las víctimas

a un plan integral que contenía el mapa de la memoria intensificar los homenajes y reconocimiento a las víctimas del terrorismo el decreto a otras víctimas

la educación en el sistema público el instituto de la memoria y la convivencia el memorial de víctimas del terrorismo que también impulsamos conjuntamente con el gobierno de españa tal como se recoge en la ley de víctimas del terrorismo en la ley de reconocimiento y reparación de las víctimas del terrorismo aprobado por este parlamento entendíamos esa política de memoria como una política integral que contaba con diversos instrumentos

y especialmente desarrollar una política de memoria que tuviera como objetivo dejar claro que nunca hubo ni hay ni habrá justificación para las actividades terroristas que la memoria

de la convivencia la paz y la libertad y por lo tanto a la deslegitimación de la violencia y que

tiene que tener como objetivo fundamental deslegitimar el terrorismo y reforzar el estado de derecho y la convivencia integradora de toda la ciudadanía

tiene que ser una herramienta fundamental para la deslegitimación ética política y social del terrorismo

en el congreso de los diputados se aprobó la ley de reconocimiento y protección integral de las víctimas del terrorismo en la que se establecía que

de reconocimiento y memoria a las víctimas del terrorismo

en esta ley es decir a las víctimas de eta a las víctimas del gal

a todas aquellas que están incluidas en esa ley a partir de ahí desde el gobierno vasco entendiendo que este era

impulsamos con el gobierno de españa un protocolo de colaboración para que este centro tal como se establecía en esta ley

se establecía en dicha ley empezamos a trabajar en un protocolo que

en un acuerdo en el que ambos gobiernos se comprometían a impulsar este memorial y en concreto se creó una comisión paritaria entre los dos gobiernos

todo el procedimiento reglamento de funcionamiento órganos que tenían que gestionar este memorial incluso se empezó a discutir la ubicación desde que nos marchamos del gobierno ninguna noticia hubo respecto al avance de este proyecto tan importante para asentar la memoria y la convivencia y también para que sea

del terrorismo no tuvimos ninguna información reclamamos esta al gobierno vasco al nuevo gobierno vasco y la respuesta que se nos dio es que no había ninguna noticia por parte del gobierno de españa para el impulso de este proyecto insisto tan importante estábamos sorprendidos no entendíamos que un gobierno

que son tan sensibles y tan cercanos a las víctimas del terrorismo y que tanto hablan de víctimas del terrorismo lleven tanto tiempo sin tomar iniciativas y concretar insisto un proyecto de memorial de víctimas del terrorismo que tendría que ser ya

por todo ello y entendiendo que ha pasado un tiempo más que suficiente y que por lo tanto hay que recuperar

para reclamar al gobierno de españa en primer lugar que inmediatamente ponga en marcha los mecanismos necesarios y las decisiones políticas para que se pueda

sacar adelante este proyecto y recuperar el tiempo perdido y también para que

de acuerdo con los protocolos firmados siga colaborando con el gobierno de españa para que este memorial sea una realidad lo antes posible hemos alcanzado una enmienda transaccional que recoge estos dos objetivos insisto que de forma inmediata el gobierno de españa ponga en marcha las medidas necesarias para abordar este proyecto previsto en la ley de víctimas del terrorismo aprobado por el congreso de los diputados y que el gobierno vasco

pasada legislatura continúe trabajando para que este memorial sea una realidad lo antes posible en euskadi quiero agradecer

también la manifestación de voto a favor del partido nacionalista vasco que así me lo ha transmitido cuando le hemos comunicado la posibilidad de transacción dado que no tenía enmienda y espero que además de la cámara entienda que este es un proyecto en ese marco de política de memoria integral en un marco en el que pretendemos sacar adelante políticas que vayan

gracias señora presidenta arratsalde on guztioi buenas tardes señor lehendakari

muy brevemente porque mi intención es la de aportar también a través de esta intervención reconocimiento algo que supone este centro nacional

este centro trae causa del artículo cincuenta y siete de la ley veintinueve barra dos mil once el veintidós de septiembre ley de reconocimiento y protección integral de las víctimas del terrorismo tal y como se ha dicho también en dicho precepto se mandaba al gobierno la constitución del centro memorial cuya cede estará en la comunidad autónoma del país vasco el mandato legal

de víctimas del terrorismo de toda españa el compromiso manifestado por el gobierno de españa es llegar a un acuerdo y un consenso básico con el gobierno tal y como manifestó el ministro de interior en el senado el diecinueve de junio del año

es decir el mandato legal se dirige al gobierno de españa que es el que debe constituir dicho centro con lo que no sería necesaria la colaboración ni tan siquiera el consenso con el gobierno vasco es más dicha colaboración podría extenderse

puesto que el terrorismo como ustedes saben ha azotado en toda españa por lo tanto la colaboración con el gobierno vasco

innecesaria como bien acabo de decir pero conveniente en el clima de consensos que debe de guiar a cualquier gobierno también en este caso al gobierno de españa y al gobierno vasco y siempre además desde la lealtad entre ambas instituciones

en una materia tan sensible como esta conviene comenzar recordando señorías que la creación y puesta en marcha

es un acto de decencia democrática las víctimas

conmigo son un ejemplo de resistencia democrática de civismo de compromiso social y de respeto a la ley

de cualquier sociedad democrática ya desde la antigua roma los emperadores para eliminar a sus enemigos

pero cuando querían ir más allá y acabar con ellos definitivamente utilizaban

su exterminación definitiva acabando también con su memoria por eso es imprescindible que las víctimas participen activa necesaria

vivido que participen en la construcción también de nuestra propia memoria

la tergiversación la manipulación para ello el terrorista suele usar interpretación del hecho que en realidad hace desaparecer a la víctima como víctima porque

y por lo tanto habría sido una cuestión justificada el discurso legitimador del terrorismo es devastador

es devastador para quien ha sufrido la acción directa del terrorismo es decir para la víctima pero es devastador también para la democracia

una tendencia autodefensiva a pasar las páginas amargas con rapidez lo que ha ocurrido no se puede olvidar

para que nunca jamás vuelva a ocurrir señorías nadie muere

pero la indiferencia es tan dura como el olvido ni debemos ni podemos ni queremos olvidarnos

no hay sociedad democrática decente que pretenda por acción

las medias verdades o las equidistancias culpables que terminen por contribuir a la mala memoria o lo que es lo mismo contribuir al olvido no puede

si dejamos de tener presente hasta qué punto las más graves violaciones de nuestros principios fundamentales pueden poner en peligro la existencia de nuestra democracia

pasado pero lo que es peor nos podemos quedar sin futuro por eso este centro a nuestro juicio

un futuro democrático y sano un futuro sobre bases

de reconocimiento de memoria de justicia por eso el grupo parlamentario popular se ha sumado a través de esta enmienda de transacción a instar al gobierno de españa a que impulse la materialización del centro nacional para la memoria de las víctimas del terrorismo y lo hacemos

con la tranquilidad de saber que en esa tarea está como quizás algunos de ustedes ya sepan

se produjo una reunión entre representantes del ministerio del interior del gobierno de españa y representantes del gobierno vasco como ustedes quizás también sepan ya

un proyecto de real decreto para la creación de un real patronato para el centro para que se retomen los trabajos pero nos sumamos

al impulso que esta proposición no de ley y más concretamente la enmienda de transacción plantea y nos sumamos sobre todo a que estos proyectos ya iniciados se finalicen

cuanto antes sin más demora muchas gracias

gracias presidenta buenas tardes a menudo

que una de las primeras iniciativas que planteó upyd en este parlamento allá por el año dos mil nueve fue una iniciativa que consistía en instar o pretender instar al gobierno de españa

que tuviera como objetivos fundamentales algunos de los que aquí se han enunciado la memoria de los hechos ocurridos la memoria de la dignidad de las víctimas del terrorismo suelo recordar a menudo que allá por el año dos mil nueve upyd planteó esta iniciativa

del señor loza parlamentario socialista en tratar de posponer el debate de esa iniciativa porque había que esperar a que hubiera el mayor consenso posible nosotros efectivamente esa iniciativa la pospusimos en varias ocasiones y creo que incluso no se llegó ni siquiera a debatir no lo recuerdo exactamente pero creo recordar que ni siquiera se llegó a debatir pero en todo caso

era instar al gobierno de españa a poner en marcha un centro memorial de las víctimas del terrorismo como en otros lugares se había hecho y se ha hecho en todo caso

ahora sí hay un acuerdo unánime entre los partidos políticos democráticos de esta cámara para proponer instar al gobierno de españa que cuanto antes se pueda poner en marcha este centro

muy necesario parece evidente que es de justicia que las víctimas del terrorismo y toda la sociedad democrática

el dolor y el horror que ha supuesto que durante más de medio siglo en euskadi hayamos tenido que soportar y sufrir el más execrable sistemático y continuado ataque a los derechos humanos a la dignidad y a la libertad de los ciudadanos

asesinados extorsionados perseguidos y atacados por defender sus ideas este centro en nuestra opinión tiene que ser también un referente en la educación

y un lugar para la defensa del estado de derecho y en definitiva de la propia democracia pensamos que tiene que ser un referente para la deslegitimación

de la historia criminal de eta de sus ideas y de las ideas de aquellos que la sustentaron y la siguen justificando y siguen sin condenar a día de hoy por eso consideramos que es urgente que se adopten ya las decisiones necesarias para ponerlo en marcha

cuanto antes porque en esta sociedad tenemos como asignatura pendiente esa deslegitimación del terrorismo y en particular de la historia y de las ideas

el grupo popular y upyd coincidimos en la necesidad de construir un centro memorial para las víctimas del terrorismo y nos gustaría también contar

que entiendo que efectivamente va a ser así que va a apoyar esta enmienda de transacción

no podemos esperar nada bueno en relación a este asunto por parte de ehb leyendo su enmienda queda una vez más claro donde están con los verdugos e intentando diluirlo todo en esa farsa que denominan conflicto político

mezclarlo todo y evitar que se recuerde a las víctimas del terrorismo nosotros no admitimos que se pretenda diluir

eufemismos de conflicto político o bandos enfrentados o en esa idea de pretender defender esa falaz del conflicto político en la enmienda eh bildu habla de una iniciativa diseñada en función de los intereses del legislativo y del ejecutivo español

y prioridades de la sociedad vasca falso es una iniciativa que pretende defender la verdad de los hechos ocurridos la memoria de las víctimas del terrorismo y la propia democracia esto es lo que pretende esta iniciativa y es lo que se pretende que sea este centro memorial de las víctimas del terrorismo

a que abandone la gestión del centro comercial memorial para las víctimas del terrorismo

esto precisamente porque no quiere defender la verdad de los hechos ocurridos manipularlos ni quiere reivindicar la memoria de las víctimas del terrorismo sino enterrarla nosotros queremos justo lo contrario defender la memoria

recordar los hechos ocurridos recordar la verdad de la historia recordar la verdad de lo que ha ocurrido en euskadi y en el resto de españa y poner también las bases

también para defender los postulados democráticos que sirva para defender las instituciones democráticas

la convivencia entre ciudadanos que piensan distinto pero que en todo caso están convencidos de que vivir en democracia es lo mejor que les puede ocurrir

a eh bildu no le gusta la verdad ni la memoria solo le gusta la manipulación y la tergiversación de la historia y es por esto

enmienda transaccional que hemos propuesto ni les gusta nuestros argumentos expuestos

para las víctimas del terrorismo efectivamente hemos llegado a una enmienda transaccional que espero que cuente también con el apoyo del grupo nacionalistas vascos como creo que va a ser

instando al gobierno de españa a retomar de forma inmediata los trabajos para la puesta en marcha del centro

o que se han pospuesto en el tiempo creo que sería también conveniente instar al propio partido popular vasco e incluso a la propia presidenta arantza quiroga a que lo transmita directamente al partido popular nacional y al gobierno de lo que efectivamente estamos pidiendo a día de hoy creo que evidentemente el partido popular puede hacer también esta labor el partido popular vasco puede hacer esta labor de

insistir ante el gobierno de españa de la necesidad de poner en marcha cuanto antes este centro memorial nosotros habíamos presentado una enmienda de totalidad de dos puntos lo cierto es que es esta enmienda de totalidad en cada uno de los puntos instaba al gobierno de españa porque tal como se ha dicho pensamos que es el gobierno de españa el que tiene que garantizar y poner en marcha este centro memorial de las víctimas del terrorismo

añadíamos que dicho centro se ubique en la localidad

esto no se ha incorporado a la enmienda de transacción evidentemente

no pretende ser quien decida dónde va a estar finalmente este centro memorial de las víctimas del terrorismo pero nos parecía conveniente al menos señalarlo en nuestra enmienda

como un lugar emblemático como un lugar que representa la rebelión

contra eta por eso lo hemos reflejado en nuestra enmienda digamos que como una reivindicación particular pero también suponiendo que el resto de partidos políticos quieren dejar abierto la ubicación

de las víctimas del terrorismo en fin estamos satisfechos con la enmienda transaccional que hemos firmado y esperamos que sirva para que

y cumpla esos objetivos que los demócratas hemos defendido siempre seguimos defendiendo a día de hoy gracias eskerrik asko maneiro jauna

erreferentzia bakar bat jasotzen da el centro nacional para la memoria de las víctimas del terrorismo tendrá su sede en la comunidad autónoma del país vasco

talka egingo dutenak dos instrumentos memorialistas que se presentan en esta misma cámara en un breve plazo de tiempo lo cual nos obliga

a poner en contraste uno con otro mientras

el trabajar la verdad la justicia la memoria de todas las víctimas de la violencia el otro nos trae una fotografía parcial de ellas

en base a la visión de las fuerzas políticas aquí hoy representadas el otro es teledirigido a distancia mientras uno se pone como meta una convivencia democrática el otro introduce el esquema

no no es lo que necesitamos en este país eztabaidatu genuenean areto honetan memoriaren institutua

también quiero traer un argumento que empleó el señor sémper en la discusión del instituto de la memoria

se triplican recursos para una misma tarea en medio de una crisis económica sin precedentes y cuando los gobiernos precisamente están elaborando planes

los objetivos a través de tres organismos diferentes un argumento que hoy considero se vuelve contra él porque si bien

se refería a tres organismos autóctonos creados desde aquí para dar una respuesta aquí hoy parece no haber problema cuadriplicar gastos trayendo otro organismo de allí y precisamente porque considero que este es el más próximo a los intereses del pp

y a los objetivos de quién responden estos organismos es

el partido de su credibilidad y de su legitimidad porque el mecanismo que hoy se nos propone impulsar es el de una visión exclusivista

volvemos a expresar nuestro más profundo reconocimiento a absolutamente todas las víctimas y su derecho a la reparación a la rehabilitación

sufrida por ellas no se vuelva jamás a repetir contra nadie y en ningún lugar velamos porque así sea para todas las personas

que hayan sufrido la violencia sea esta de un signo o de otro de un agente estatal o de un agente extra estatal de todas

de los derechos ante el mismo daño sufrido tenemos que establecer el futuro sobre los principios de justicia verdad y memoria es por eso que no queremos un relato parcial no queremos un relato basado en vencedores y vencidos

más aún la labor de la convivencia democrática que tenemos que instalar en este país no es este nuestro esquema

que se vean relegadas de sus derechos a ser reparadas y rehabilitadas no renegamos de la política para reestablecer los principios de normalidad política

una última reflexión al hilo de las primeras palabras del señor ares que decía que al principio de su intervención decía que la legislatura pasada

pues bien esta última reflexión tiene mucho que ver con estas palabras del señor ares con las palabras digo que nos gustaría se viesen acompañadas también por los hechos la paz y la convivencia en este país exigen consensos amplios

esfuerzos para construir y no intentos de separar y tampoco de paralizar para eso es necesario mantener espacios de diálogo protegidos del ruido mediático

lo hemos dicho siempre cuando estuvimos en labores de gobierno cuando pasamos a la oposición y lo reiteramos hoy desde la responsabilidad otra vez del gobierno lo décimos

en este sentido una ponencia parlamentaria es el instrumento más eficaz para tratar estos temas y avanzar en los consensos lo fue durante años lo fue la ponencia de víctimas y la ponencia de paz y convivencia en la legislatura pasada no entendemos

lo que ha sido deseable y defendido por muchos hasta ahora deje de serlo cuando estamos tocando por fin la paz definitiva en este país con las yemas de los dedos nada más gracias

a la iniciativa socialista a través de la enmienda transaccional también a upyd y señor iturrate le puedo asegurar que los socialistas seguimos comprometidos con el dialogo y la búsqueda de acuerdos

para conseguir acuerdos es renunciar a la defensa de los principios básicos que siempre hemos defendido y a la exigencia permanente de que aquellos que tienen que recorrer un largo camino lo sigan recorriendo porque estamos convencidos

que ha dado resultado y que tiene que dar resultado en el futuro señor sémper usted ha dicho que

tiene que ser impulsada por el gobierno de españa el gobierno de españa ahora es un gobierno del pp el gobierno del señor rajoy yo no voy a entrar

con usted ni por supuesto en discursos floridos pero sí voy a pedirle que haga lo necesario para recuperar el tiempo perdido para pasar de los discursos a los hechos y para

necesario sea una realidad lo antes posible y por lo tanto le emplazo a usar toda la influencia que ustedes tienen para que además de la petición que mayoritariamente vamos a hacer desde el parlamento el memorial sea una realidad lo antes posible

mire es una prioridad de la inmensa mayoría de la sociedad vasca y por supuesto responde a las exigencias y las prioridades de una inmensa mayoría de las victimas del terrorismo

porque el medidor más exacto para saber lo que quiera la sociedad vasca es medir qué deciden qué apoyan quienes los representamos y hoy

estamos de acuerdo en reconocer que el memorial es absolutamente necesario y por lo tanto habrá una minoría que considere que no es necesario

que no pretenda representar a la mayoría social del país o a las prioridades del país usted representa

y yo comprendo que un partido usted mismo

han amparado y justificado la violencia terrorista pretendan que no haya memoria porque eso probablemente

recordar el daño y el sufrimiento que el terrorismo ha causado en este país y también que se olvidara las responsabilidades que ustedes tienen en el apoyo amparo y justificación al terrorismo pero

tendrán que reconocer y asumir la responsabilidad de las equivocaciones de su pasado tarde o temprano tendrán que asumir que asesinar

que coaccionar que matar nunca ha tenido tiene y tendrá justificación

y que tenemos que asentar la convivencia sí pero sobre memoria verdad y justicia y sobre principios éticos y democráticos básicos que ustedes hasta ahora

que forman parte esos principios básicos del acta fundacional

y no hay que confundir las cosas el memorial de victimas del terrorismo es un gran edificio

como hemos visto en muchos países en alemania en chile en italia en la ex yugoslavia el instituto de la memoria de la convivencia es un organismo

de memoria y de convivencia y ambos tienen objetivos complementarios y responden a una política integral de memoria

de convivencia el problema es que ustedes siguen queriendo que trabajemos desde la desmemoria para no tener que asumir las responsabilidades de su pasado

señora presidenta señor arzuaga no deja de sorprenderme usted con alguno de sus argumentos

no quiero dejar de referirme a ellos usted se lamentaba y hacía referencia que la única implicación o referencia que se hace en la ley referencia para la creación de este centro memorial al país vasco era su ubicación

yo voy a decir algo con mucha crudeza le parece poca la referencia

y a los vascos le parece poca la vergüenza que hemos tenido que soportar los vascos porque hubo y existe una banda de terroristas que decía asesinar en nuestro nombre para liberarnos

le parece poca la referencia que ha hecho eta a lo largo de su macabra historia

pesa como una losa sobre nosotros la historia de eta pesa como una losa de vergüenza sobre los vascos

porque siempre sus asesinatos han llevado nuestro apellido el apellido de euskadi aquel que decía que asesinaba en nuestro nombre para liberarnos de no se sabe qué y la única brecha que se abre y se agranda señor arzuaga con cada una de sus intervenciones

esa es la única brecha con la falta de sensibilidad y de entendimiento de la realidad que usted demuestra con cada una de sus intervenciones mire

veintiuno asesinatos en el año mil novecientos ochenta y siete en un supermercado en hipercor veintiuno asesinatos doce asesinatos en el año mil novecientos ochenta y seis con una bomba en la plaza de la república dominicana once asesinatos entre ellos cinco niños

tres coches bomba en madrid frente a tres colegios en el año mil novecientos noventa y uno en el que hay un asesinato

una niña pierde sus dos piernas diez asesinados entre ello cuatro niños con una bomba en la casa cuartel

con un coche bomba en la parte vieja de madrid siete asesinados y veinte heridos en la calle lópez hoyos de madrid con dos coches bomba

civiles de la armada asesinados con un coche bomba en el barrio de vallecas de madrid un chaval de veintinueve años

asesinado a cámara lenta dejado tirado en un bosque moribundo con las manos atadas y con dos tiros en la cabeza

blanco garrido un

su conductor su escolta y un conductor de autobús que pasaba por allí

de euskal herria todos y cada uno de esos hitos amparados y justificados por la izquierda

como para que ahora usted venga a decirnos lo que necesitamos o no necesitamos los vascos

y con la desfachatez que les caracteriza nos diga que la sociedad vasca no merece hacer y no obligada a hacer un reconocimiento a las víctimas del terrorismo tenemos una deuda desde luego con la sociedad

y con la sociedad española tenemos una deuda con nosotros mismos como vascos con la sociedad vasca con la sociedad española

del terrorismo y esta sociedad desde luego después de oír sus intervenciones necesita imperiosamente hacer permanentemente una apología de la democracia y un enaltecimiento de la víctimas del terrorismo sobre todo después

dos modelos complementarios es una forma de verlo yo veo que son dos modelos contradictorios nos hablan de responsabilidad y señalan a esta bancada pero es que nosotros queremos hablar de la responsabilidad absolutamente de todos señor ares de todos memoria toda la memoria completa

le diga que lo reconocemos pero que no es el listado definitivo que no es

con esta iniciativa se nos hurta la fotografía completa y lo que es peor se propone idolatrar esa fotografía

eso es decolorar la deuda que algunos todavía tienen

con la justicia y con la memoria nuestra posición con respecto al instituto de los derechos humanos la memoria y la convivencia fue clara

pero estamos dispuestos a trabajar a llevar nuestras propuestas a hacer nuestras enmiendas para que ese proyecto salga adelante la posición del pnv y del pse por otra parte

que se oponen a la propuesta de ley de ese instituto que emanaría de este propio parlamento

a imagen de la realidad social de este país y prefieren incorporar otra que viene desde la distancia es esa la posición que nosotros

empieza a estar muy harta de todos nosotros de esta obsesión

a repetir y a escuchar los mismos reproches las mismas proclamas en una obsesión de estar continuamente

en las trincheras de cada uno me sorprende que al señor sémper

le recuerdan al día de la marmota precisamente este tema

con las mismas descalificaciones con los mismos reproches no le recuerde a este día y es que yo creo que unos sin querer dar el paso al futuro bien sea por vértigo

por cálculo electoral y otros queriendo correr al futuro sin leer el pasado sin leer las páginas de la historia

que por acción u omisión se han tenido ante toda esa barbarie en todo caso

y el señor maneiro apuntaba un dato que yo creo que es revelador él decía que en diciembre del dos mil nueve presentó a la primera iniciativa

a la construcción de un centro memorial de las víctimas del terrorismo y efectivamente estuvo durmiendo el sueño de los justos durante prácticamente toda la legislatura y es que éramos mayoría en esta cámara quienes pensábamos que estos temas

la convivencia la memoria el respeto a las víctimas merecía

de todos los partidos políticos por mantener este tema fuera del rifirrafe político por escapar de intentar hacer ventajismo político del dolor de las víctimas lo que entonces valía esa apuesta que entonces

parece que esta legislatura cuando la violencia de eta desapareció definitivamente no sirve y yo vuelvo a lanzar esa pregunta qué ha pasado en este país

un método que era para todos valioso durante todos estos años seamos capaces de echarlo a la papelera necesitamos un espacio protegido

un lugar en el que podamos tratar estos temas fuera del rifirrafe diario necesitamos y debemos comprometernos todos con una manera más honesta de hacer política que la de en plenas negociaciones sobre asuntos tan importantes como la memoria uno utilice los altavoces

para dar respuesta al resto de partidos políticos nada más gracias eskerrik asko iturrate jauna eztabaida amaituta

gracias señora presidenta desde este grupo presentamos esta iniciativa que aunque no se insta

el objeto de la misma que es la elaboración de una normativa

y por lo tanto también para nuestra comunidad autónoma en esa necesaria e importante normativa para todos los poderes públicos en la misión de trabajar

con discapacidad finalmente hemos llegado a una enmienda de transacción entre el partido nacionalista vasco el partido socialista upyd y nosotros desde aquí quiero dar las gracias

a la transacción que además creemos que la enmienda tal y como ha quedado

y desde luego viene a completar la iniciativa original en la normativa española los artículos nueve diez catorce y cuarenta y nueve entre otros de la constitución

remover todos los obstáculos que impidan que los derechos y libertades de todas las personas sean reales y efectivos sin embargo las personas con discapacidad en ocasiones han visto sus derechos condicionados u obstaculizados y se han visto limitado

para el resto de la población estos impedimentos para el pleno ejercicio de sus derechos pueden llevar a situaciones de exclusión y corresponde como decía

que se produzcan estas exclusiones un avance relevante la materialización de los mandatos constitucionales se da por primera vez en las cortes generales en mil novecientos ochenta y dos cuando tiene entrada la ley de integración del minusválido la llamada lismi carta de naturaleza en el órgano de representación de los ciudadanos la preocupación de mejorar la situación de las personas con discapacidad carta de naturaleza que se plasma también en las distintas leyes que se han ido aprobando por los distintos gobiernos

de igualdad de oportunidades no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad que dio un nuevo impulso a las políticas de equiparación

supuso la introducción de los principios de accesibilidad universal y diseño para todos además supuso un gran cambio en la forma de abordar el fenómeno de la discapacidad al plantearlo como una cuestión de derechos humanos

esta ley se configura como un marco de referencia necesario para encauzar y coordinar la acción de los poderes públicos

de medidas de acción positiva para los colectivos en situación de desigualdad social los principios de igualdad de oportunidades

que tomó forma con la aprobación de la ley cuarenta y nueve barra dos mil siete de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades pero dichas leyes en la actualidad se van a ver afectadas por instrumentos aprobados internacionalmente así y como también recogemos en la enmienda transaccional la asamblea general de naciones unidas

aprueba la convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad

en dicha convención se consagra los derechos de las personas con discapacidad los considera

de todos los poderes públicos de garantizar el ejercicio pleno y efectivo de dichos derechos en agosto de dos mil once se aprueba en congreso de los diputados la ley veintiséis barra dos mil once

la normativa de la convención citada y da un plazo a nuestro país

sobre discapacidad y que se adaptase además a la propia convención

de seguridad jurídica y dar más claridad a la ley a las legislaciones que existían en materia de discapacidad

con efectividad mejorar las condiciones y aumentar la calidad de vida y la igualdad de las personas con discapacidad

como decía es preciso llevar a cabo una adaptación de la normativa a la convención internacional aprobada por las asambleas de las naciones unidas porque afecta esta convención a la normativa preexistente y alguna de las preescisiones legales

convención en nuestra propuesta original cuando hablábamos de adaptar es lo que queríamos decir sin embargo por parte de uno de los grupos se presentó

y como creemos que de esta forma puede quedar más claro pues en la enmienda de transacción así ha aparecido pero

un primer borrador de esta ley fue presentado el primer semestre de este año ante el pleno del consejo nacional de discapacidad

las administraciones este borrador que se presentó tiene también novedades que no tienen precedentes en nuestra normativa

y en incluir las definiciones de discriminación directa indirecta

con el fin de contemplar el marco jurídico de prohibición de discriminación en cualquiera de sus manifestaciones es verdad que se presentó

por ello desde aquí lo que le solicitamos al gobierno de españa es que siendo importante siendo importante la aportación del sector de todas las asociaciones

la ley de una vez por eso consideramos importante que antes del treinta y uno de diciembre esta ley esté ya presentada y aprobada en esa misma reunión con las asociaciones del sector a las que he hecho referencia en la que se presentó el borrador y en el marco de las actuaciones de la estrategia española de discapacidad dos mil doce dos mil diez

marco sobre el que se asentarán todas las actuaciones políticas en materia de discapacidad para los próximos años los principales objetivos de dicho plan serán

impulsar la empleabilidad de las personas con discapacidad reducir la tasa de abandono escolar y promover la participación de todos los ciudadanos con discapacidad en la vida pública y política

por supuesto que tanto la aprobación de la ley como la aprobación de este plan se harán con respeto a las competencias de las comunidades autónomas y así lo hemos recogido también en la enmienda de transacción colaboración y coordinación que se realiza en el seno del consejo territorial de servicios sociales y dependencia

este plan que se está viendo con el sector está siendo sujeto de múltiples aportaciones y

que el plan se apruebe y se ponga ya en marcha por ello desde aquí como además tenemos un acuerdo entre cuatro grupos y lo que

es que el gobierno de españa lo que lleve a cabo es la aplicación de la ley general de discapacidad porque dará una mayor seguridad jurídica porque supondrá un avance importante en temas hasta ahora

y que por fin aunque ya se llevan llevando a cabo desde hace muchos años acciones en favor de las personas con discapacidad pero las dificultades y obstáculos para el pleno ejercicio de sus derechos que todavía hoy en día existen puedan ser si no eliminadas desde luego

firmada por la práctica totalidad de los grupos se incluyen todas nuestras reivindicaciones también lo que proponíamos nosotros en nuestra enmienda de totalidad creo que ha quedado una enmienda de transacción

deberíamos comenzar por incluir y cumplir las cláusulas sociales en la contratación pública incluir y sobre todo cumplir

adostasun arloak jorratzeko pero claro también tenemos muy claro que nuestro trabajo partirá desde el consenso con las asociaciones

sobre nuestra propia realidad y nos comuniquen nos hagan partícipes de los impedimentos dificultades e incumplimientos

en relación a este asunto en nuestra enmienda a la totalidad también instábamos al gobierno a fortalecer unos servicios públicos que no admitan ningún tipo de recorte

que los recortes en los servicios públicos discriminan doblemente a los colectivos más vulnerables y los recursos que necesitan las personas con diversidad funcional

y cuando hablamos de derechos deberíamos descontextualizarlo y no ligarlo a partidas presupuestarias

de crisis pero parece que este asunto en la enmienda transaccionada no se menciona

no de ley original que presentó el grupo popular vasco el catorce de febrero y que debatimos hoy en esta cámara es el mismo que se debatía el veintiséis de febrero en la comisión de discapacidad del congreso por cierto que desde febrero hasta hoy ya han pasado ocho meses y la nueva ley general de discapacidad aún no se ha presentado no hace falta

para prever que el partido popular presentará el proyecto de ley el próximo tres de diciembre aprovechando la celebración del día internacional de las personas con discapacidad

pero la cuestión es que la discapacidad no es patrimonio de nadie

el grupo socialista por supuesto apoya esta iniciativa lógicamente porque se trata de un mandato legal que fue aprobado en el congreso de los diputados por todos los grupos en la pasada legislatura en la pasada legislatura me refiero

a pesar de ello quiero señalar dos cuestiones en primer lugar que la ley de adaptación normativa a la convención internacional sobre los derechos de las personas

otorgaba al gobierno el plazo de un año desde la entrada en vigor de la propia ley para la elaboración y aprobación del texto refundido

la liondau y la ley de infracciones y sanciones de dos mil siete

hasta el treinta y uno de diciembre del dos mil trece a través de una enmienda al proyecto de ley de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios

por el cambio de legislatura por la complejidad en la elaboración y por la voluntad de consultar al tercer sector las comunidades autónomas y demás órganos pertinentes lo que nos preocupa es que este asunto sea realmente una prioridad del ministerio de sanidad y servicios sociales

para pedirle a su gobierno al gobierno del partido popular en madrid que cumpla la ley y el mandato que ya dio la comisión de discapacidad del congreso el veintiséis de febrero de este mismo año

y desde el mes de febrero los populares hubieran presentado el proyecto de ley mientras tanto el gobierno del partido popular ha estado entretenido en recortar derechos de las personas con discapacidad que les están afectando y mucho se lo aseguro señora llanos y mucho

para recortar derechos reducir financiación y desproteger a las personas con discapacidad

por eso el grupo socialista en el congreso está muy pendiente

no obstante como este tema lo estamos debatiendo y en su momento hubo un período para presentación de enmiendas los socialistas vascos planteamos dos puntos en la enmienda que presentamos a la propuesta original y agradecemos por supuesto que hayan sido incorporadas en la enmienda transaccional esos dos puntos dicen el parlamento vasco insta al gobierno de españa

políticas de no discriminación y de acción positiva para que las personas con discapacidad

asimismo instamos al gobierno de españa a seguir desarrollando las actuaciones y medidas estratégicas que recoge la estrategia española de discapacidad dos mil doce dos mil veinte y a que se articule y concrete el plan de acción dos mil trece dos mil quince buscando el acuerdo respecto a su contenido

autónomas termino mi intervención esperando que cuando esta nueva ley general de discapacidad se apruebe no suponga un recorte de derechos

y que exista un clima de consenso de diálogo y se tengan en cuenta por supuesto las aportaciones de las entidades y también las aportaciones de los grupos
parlamentarios muchas gracias eskerrik asko sarasua andrea

es cierto que hace un tiempo hubo reivindicaciones en el sentido de unificar y actualizar la legislación estatal vigente en materia de discapacidad

justificación de la pnl que estamos debatiendo pero es necesaria una nueva ley

en la ley de dependencia creemos que sería mucho más efectivo cumplir la legislación actual en su integridad más que aventurarnos en la promulgación de una nueva ley

dichas reivindicaciones surgieron ante el temor de que la discapacidad pudiera ser absorbida por la problemática de las personas mayores y en este sentido hubo movimientos parados en la actualidad insisto que pretendían una diferenciación entre ambas realidades

tememos que en este caso pretendan más de lo mismo por eso

única y exclusivamente dirigida al gobierno de madrid pretendemos con la enmienda presentada en su momento y que hemos transado salvaguardar nuestro ámbito competencial

creemos que si madrid entiende que en su ámbito competencial es necesario unificar y actualizar la legislación estatal vigente y promover una ley general de discapacidad que lo hagan

pero si vuelven a caer en la tentación de la recentralización sin respetar las competencias exclusivas que nuestras instituciones tienen en esta materia nos encontrarán oponiéndonos a la misma con todos los medios a nuestro alcance así mismo entendemos imprescindible abrir canales de diálogo constantes con las asociaciones más representativas del sector previamente a la redacción del borrador a fin de que sean escuchadas sus reivindicaciones desde el primer momento y eso se recogía también en nuestra enmienda y bueno en los borradores y que ha habido conversaciones con diferentes asociaciones representativas del sector y entrando en nuestro ámbito competencial nunca nos ha parecido necesario diferenciar al colectivo de la discapacidad de otros colectivos personas mayores personas en riesgos de exclusión ni tampoco

específica y diferenciada pero es que además tampoco ha sido demandado tenemos una ley de servicios sociales integradora y normalizadora por lo que en euskadi no vemos la necesidad de aprobar una ley que discrimine positivamente a ningún colectivo en este caso al de la discapacidad porque por esa misma regla podríamos promover leyes para las personas mayores para las personas en riesgo de exclusión etcétera amaitzeko

es verdad que nosotros presentamos esta proposición aquí en febrero que se había presentado también

en el congreso de los diputados y es verdad que la iniciativa que se presentó en el congreso de los diputados por parte del grupo popular

para intentar adelantar ese plazo del treinta y uno de diciembre por eso nosotros en nuestra iniciativa original no habíamos puesto el plazo del treinta y uno de diciembre lo que pasa es lo que le he dicho antes ha habido muchas conversaciones

en las que cada uno a querido hacer su aportación y que por lo tanto en ese intento de recoger los acuerdos de todos es por lo que ha tardado pero de todas formas señora sarasua lo de ver la paja

es algo consustancial porque yo en la anterior legislatura que solamente estuve

pedí en varias ocasiones que se trajese la ley de vivienda

que se elaborase la rpt de lanbide y el gobierno del lehendakari lópez no lo llego a traer el plan de empleo sí con bastante retraso luego

y precisamente ustedes cuando han estado gobernando de esos retrasos también saben algo y dice que hemos estado entretenidos

en introducir una cláusula en el nuevo fondo de liquidez autonómica entretenidos en incrementar las pensiones especificas de las personas con discapacidad entretenidos

de promoción de la autonomía personal entretenidos en suspender los desahucios para las personas con discapacidad entretenidos en introducir

priorizar el empleo de las personas con discapacidad entretenidos en apoyar el entretenimiento y el autoempleo de las personas con discapacidad y entretenidos en destinar

en las ofertas de empleo público del dos mil trece del siete por ciento de plazas para las personas con discapacidad y de crear un turno especifico del dos por ciento una cuota especifica para personas con discapacidad intelectual usted decía señora arregi que no hay que

sí pide especializaciones y esa reunificación de la normativa

que viene obligado pero que además hay que hacer una adaptación de la convención de derechos humanos que por lo tanto la ley iba mucho más allá de la elaboración de un texto refundido

que tiene menos complejidad sino en llevar a cabo una ley general de discapacidad que sí era solicitada por el sector precisamente para la introducción de una serie de conceptos nuevos que por supuesto que el sector pide muchas más cosas pero esto también para tener una seguridad jurídica que hasta ahora

instemos bueno yo a partir de ahora verdad y nos ahorramos ocho minutos sí le digo que esa primera pregunta que ustedes hacen al gobierno en todos los plenos de control

con una llamada al consejero de turno pues ya es suficiente le dan información y no la necesitan no necesitan presentar aquí nada y con relación a eh bildu pues no

había poco que acordar porque dicen que insten al gobierno no sabemos a cuál si al de aquí al gobierno vasco o al de españa

y siendo condición previa para ello el establecimiento de nuestra propia realidad por eso le digo no sé si nuestra propia realidad la realidad de euskadi porque ustedes la propia realidad siempre es la realidad de euskadi entonces

es el gobierno vasco ya le digo además de que no vamos a firmar la enmienda con usted con este contenido y además aprovechando que eso también lo ha aprovechado la señora sarasua que el pisuerga pasa por valladolid aquí cada uno viene a hablar de su libro

era solicitar que se cree un instrumento que consideramos

creemos que va a ser importante para todas las instituciones y que por lo tanto desde una institución como el parlamento vasco

al gobierno de madrid cosas que ya están haciendo como digo y como he dicho en mi primera intervención y deberían ustedes como

no están haciendo por ejemplo podían ustedes pedirle al gobierno de españa que no recortase un cuarenta y siete por ciento

proyecto de presupuestos esa por ejemplo sería una buena idea y

decirle a la señora llanos que ana mato lleva anunciando una ley general de la discapacidad en el mes de enero en el mes de febrero en el mes de marzo

en mayo en junio en julio en agosto en septiembre y hace poquito hace una semana ha vuelto a decir que la ley general de discapacidad verá la luz

pitonisa para entender que el tres de diciembre que es el día internacional de las personas con discapacidad pues veremos ese anuncio y por mi parte darle las gracias